acordarse

sí señora presidenta me da la sensación que el voto electrónico va a ser más rápido que este modelo
por lo tanto igual es cuestión de hacer un nuevo receso para pensarlo bigarrena

la resolución número dos nuestra con la enmienda técnica que hemos presentado es la que se ha votado y había una enmienda transaccional con bildu que la retiramos

la resolución número dos presentada por el partido socialista con la enmienda técnica que he presentado

una palabra mejor dicho dos es la que se ha votado y ahora

una enmienda transaccional de bildu con el partido socialista que la hemos retirado legebiltzarburu andrea